ciento ochenta y siete personas con nombres y apellidos lo que significa que aquí cada dos días una persona se quita la vida porque sufre

las unidades infantojuveniles y las urgencias han estado en muchas ocasiones saturadas desbordadas con una afluencia

y más de la esperada también con casos graves y llama mucho la atención el impacto que la pandemia está teniendo en las personas más jóvenes y sobre todo en las mujeres más jóvenes porque

neska gazteen kasuan bikoiztu egin dira elikadura portaeraren nahasmenduak se han duplicado los trastornos de la conducta alimentaria

según unicef el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre las personas jóvenes

solo son la punta porque hablamos de lo más grave detrás de todo eso subyace un impacto colectivo anabasa

eta abar eta abar modu batean edo bestean denok jasan dugu inpaktua todas hemos sufrido el impacto en mayor o menor medida pero la huella a nivel emocional está ahí el desgaste es colectivo y no nos engañemos porque sus consecuencias para muchas personas van más allá

cansancio y esto no es solo hartazgo son muchos y muchas las expertas y profesionales que apuntan que las repercusiones neurológicas psicológicas y psiquiátricas de la pandemia van a suponer un reto sanitario

que supondrá un esfuerzo sanitario durante los próximos años y están hablando de años cómo vamos

y abordar este reto nosotras hoy con nuestra propuesta planteábamos un primer paso solo eso un primer paso lehen urratsa herri erronka horri aurre egiteko

y lo planteábamos así como un diagnóstico por varios motivos

en cuanto a su metodología alude en general a realizar un análisis profundo para determinar ante cualquier situación en este caso

hechos evidencias sobre estudios y análisis ya realizados y en su conjunto nos permite juzgar mejor qué es lo que está pasando

inpaktua egon denik ez y si en ese camino el departamento de salud ya tiene hecho un recorrido pues mejor que mejor porque todo suma y todo es complementario de hecho no podríamos hacer una radiografía completa de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido sin los datos y el conocimiento del sistema público de salud

porque precisamente desde osakidetza no llegamos a atender toda la demanda en salud mental de la ciudadanía hay cientos de personas que acuden al ámbito privado fuera del sistema a gabinetes de terapeutas psicólogas psiquiatras etcétera

pero el departamento de salud no tiene toda la información porque no trata la salud mental del conjunto de la ciudadanía esto es una evidencia eta

gainditzen dugun ezinegona porque sí nos vamos a quitar las mascarillas en la calle aunque sea

la ansiedad y muchas otras cosas denbora eta artatzea

guztioi efectivamente hemos llegado a una transacción la verdad es que nuestro grupo comparte o compartía el grueso de la iniciativa original que presentó

que nos preocupa y que nos está ocupando los últimos meses a nuestra coalición tanto aquí como en el conjunto del estado y me gustaría explicar por qué

digamos el centro de la iniciativa de la propuesta y de lo que parece ser

al gobierno nosotros pensamos que en este momento la sanidad pública tiene que tener en cuenta el impacto específico específico y adicional que han supuesto

como el confinamiento el distanciamiento social la falta de socialización frustración miedo incertidumbre por la salud a los que se unen

más bajas esto ha dado lugar ahí están los datos

evolución rápida desfavorable de las demencias abusos

otros casos que podrán surgir a medio plazo como trastornos de estrés postraumáticos y mayor riesgo de conductas suicidas y autolesiones

reforzar el marco asistencial en osakidetza y adoptar acciones específicas en este ámbito

porque efectivamente se nos dirá que hay un servicio de salud

es de un diagnóstico y de un plan específico como saben ustedes unidas podemos ha presentado en el congreso una proposición de ley de salud mental esta propuesta que en realidad es similar a la que ya presentamos en el año dos mil diecinueve pero que incluye en esta ocasión

durante la pandemia en concreto el artículo treinta y cinco de la propuesta

con programas específicos para identificar patologías en salud mental o la realización de estudios de investigación que aborden tanto los síntomas de la infección como otros originados en el contexto de la pandemia bueno yo no pretendo utilizar este debate

lo que quiero es utilizarlo para mostrar la preocupación de nuestra coalición por este asunto y también para mostrar el enfoque que tenemos del mismo se trata en nuestra opinión de un gran y específico y me reitero en lo de específico

en el ámbito de la salud mental que pensamos que requiere de una acción precisamente específica como respuesta a ese impacto por eso planteamos un plan específico y para realizarlo lógicamente un diagnóstico específico y por supuesto

y bien elaborado en segundo lugar nosotros incluíamos a través de nuestra enmienda un diagnóstico que tenga en cuenta determinadas variables que me gustaría explicar por qué le damos importancia

y realidad social está demostrado que a medida que se desciende en la clase social en el nivel de estudios cuando el área de residencia posee mayor privación o son mayores las dificultades para llegar a fin de mes la prevalencia de ansiedad y depresión es mayor y los problemas de salud mental en general también los problemas de ansiedad y depresión

de salud los principales factores determinantes de estas problemáticas son de carácter socioeconómico y se sitúan más allá por lo tanto de las características individuales hay un cuadro que es muy sencillo por eso lo saco porque creo que se ve que es

un cuadro en el que podemos ver los datos de salud mental referidos a la población vasca a la población de euskadi según diferentes ejes de desigualdad social clase social nivel educativo nivel de privación socioeconómica del área de residencia y dificultad económica para llegar a fin de mes se tienen en cuenta

muy visual el porcentaje de población que no padece síntomas de ansiedad

más altas es decir que la inseguridad económica que tienen las personas con menos recursos económicos les hace sufrir más trastornos mentales y en el caso de las mujeres además más

existe por lo tanto un sesgo de género que es otra de las cuestiones que nosotros incluimos que también se debe atender de manera específica y lo mismo pasa con la edad ha comentado también ha hecho referencia a ello la señora garde donde la juventud sufre

en salud mental en este caso a raíz de la pandemia y luego una tercera cuestión que nosotros planteábamos relativa a garantizar

de las peleas no nosotros planteamos una mejor atención psiquiátrica aumentando recursos de una manera muy concreta en esta ocasión hemos planteado la mejora de la dotación de psicólogos clínicos en atención primaria es una propuesta que tal vez

explicación yo lo que voy a hacer es citar a la federación de euskadi de asociaciones de familiares y personas con problemas de salud mental que además creo que se reunieron no hace demasiado con la consejera y a raíz de aquella reunión plantearon una cosa muy concreta que yo la voy a citar con los mismos recursos no se puede dar respuesta

si no es a costa de aminorar la calidad de la atención en otros servicios igualmente necesarios estas eran sus palabras que desde luego nuestra coalición comparte y en base a ellas hacemos planteamiento concreto una propuesta concreta esta sobredotación de psicólogos en atención primaria que está relacionada y por eso la planteamos con las propias carencias

previamente a la pandemia el ratio profesionales personas usuarias en los servicios

las personas con enfermedad mental requieren de un tiempo de atención profesional y esto pensamos que no se está teniendo en cuenta al impacto de la pandemia esta situación está conllevando una merma en la calidad de la atención prestada porque supone además una sobrecarga de trabajo para las y los profesionales actualmente la atención primaria

con los psicólogos suficientes y esto pensamos que hay que poner también medidas para solucionarlo porque esto incrementa

de la red pública pero también de la red privada y también produce un efecto que es el de la hipermedicalización de este grupo de pacientes pensamos que si queremos una mejor salud mental necesitamos lo primero de todo mejorar el diagnóstico de salud mental de la población en este caso de manera específica en relación

la pandemia y esto pasa entre otras cosas por mejorar los diagnósticos

para esto hace falta aumentar el tiempo que cada médico de atención primaria puede dedicar a cada paciente para que los facultativos tengan el tiempo suficiente de entender bien qué les están planteando

hacen falta más profesionales la falta de profesionales y por tanto de ese tiempo destinado a pacientes facilita como decía la prescripción de psicofármacos

impide un adecuado abordaje de las causas reales subyacentes a los problemas de salud mental

es evidente que la situación actual está teniendo importantes efectos sanitarios sociales económicos laborales y personales que afectan de forma directa e importante a la salud mental

como de quienes se encuentran en riesgo de desarrollarlo a raíz de la pandemia como consecuencia de este impacto los niveles de ansiedad miedo

se han extendido e incrementado en los últimos meses y por eso pensamos que se precisa una atención concreta específica

y como yo creo que es lo que plantea la iniciativa besterik ez eskerrik asko

el impacto sobre la salud mental del covid diecinueve es evidente de la pandemia ha tenido impactos

de los ciudadanos vascos y esto es algo innegable e indudable en primer lugar el confinamiento y las medidas de aislamiento que supusieron limitaciones de derechos fundamentales que sí eran necesarias en ese momento este tipo de limitaciones para

asistencial y con el objetivo también de parar la transmisibilidad del virus

estas medidas han afectado claramente a nuestro día a día

más vulnerables como pueden ser las personas mayores o las personas que viven solas a esto hay que unirle también el escenario de incertidumbre en el que

y sobre todo me quiero acordar y quiero hacer una especial referencia a aquellas personas que han podido perder su puesto de trabajo que han estado en una situación económica y de empleabilidad de dificultad yo creo que

ha sido muchísimo más severa sin duda han aparecido nuevas patologías y algunas de las existentes también han podido verse

muchos episodios relacionados con la ansiedad con el miedo con la soledad con el estrés con el insomnio que están ahí y que sobre todo como digo

de la situación y de los efectos emocionales de la pandemia creemos conveniente en este sentido conocer las causas y que se realice un análisis exhaustivo sobre esta situación y cómo ha podido incidir en los diversos colectivos y en las personas como se ha dicho aquí

hay asociaciones como fedeafes que ya bueno pues ha solicitado más inversión en lo que es salud mental

una asignatura pendiente y sin duda que muchas de las cuestiones o deficiencias que podían rodear a la atención de salud mental en el ámbito de la atención primaria han quedado puestas de manifiesto de relieve a lo largo de toda esta

una enmienda a la totalidad hablando de la realización de un análisis y en ese sentido una vez que se realizara dicho análisis

la red de salud mental en la comunidad autónoma del país vasco añadíamos un segundo punto que en principio no se ha incluido en la enmienda de transacción

iniciativa pero que también lo hemos abordado en alguna otra iniciativa y en algún otro debate con la señora kortajarena a propósito también de personas en esta situación que se quedaban al margen de la

y hablábamos de la deficiencia o del déficit de plazas de enfermedad mental en las residencias en el ámbito foral y en ese sentido nosotros pedimos que se aumente la financiación de las plazas de enfermedades mentales en los convenios de gasto sociosanitario con el objeto de dar cobertura económica

más bien porque hemos preferido centrar la enmienda de transacción en lo que es el análisis las medidas y nosotros

la enmienda de transacción suscrita porque

y en cuanto a la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno partido nacionalista vasco y partido socialista

hablar de que se insta al gobierno vasco a que los servicios de salud mental

emocionales y particularmente sobre la salud mental que la pandemia pudiera haber ocasionado qué menos que los servicios de salud mental estén siempre vigilantes no ahora sino siempre creo que

no tan conservadores y haber sido un poquito más ambiciosos

creo que merece una atención específica a las consecuencias que ha tenido en la salud mental la situación de la pandemia y sobre todo en los colectivos

vulnerables hemos conocido numerosos informes creo que además muy prolijos muy exhaustivos y también las propias tasas de suicidios que nosotros mañana

también ha tenido su incidencia en el incremento de suicidios por lo tanto son realidades que están ahí que hay que abordar y que no se les puede dar la espalda y que

ser breve yo creo que todos compartimos que aunque la crisis provocada por la covid diecinueve es en primer lugar una crisis de salud física también ha tenido una importante incidencia en el bienestar emocional de cada uno de nosotros algo que todos hemos sufrido la primera situación de desconcierto generalizado el miedo a lo desconocido y el impacto

en nuestra propia percepción de la situación importante y esto se unió además a la limitación de nuestras relaciones sociales como se ha comentado

y de estrés pero junto a esta afección generalizada lo cierto es que la incidencia ha sido mayor en poblaciones vulnerables personas ancianas

las consecuencias económicas y laborales de la pérdida de sus empleos de una manera u otra

hemos coincidido en afirmar como un hecho esa incidencia de la pandemia en nuestra salud mental y lo cierto es que si así lo hacemos es porque existe una importante aceptación de esta premisa desde los primeros momentos de la pandemia

vinieron alertando de estos riesgos y lo cierto es que diferentes organismos internacionales vinieron a ponerlo de relieve realizando recomendaciones para abordar esta cuestión

una de las principales y primeras aportaciones fue la realizada en mayo del año dos mil veinte en el informe de las naciones unidas titulada la covid diecinueve y la necesidad de actuar en relación con la salud mental

lo cierto es que más allá de apuntes generales y recomendaciones abstractas el estudio del impacto de la pandemia del covid diecinueve en nuestra salud mental y bienestar emocional ha adquirido una relevancia importante llegando a contar en estas fechas ya con importantes estudios a nivel internacional europeo y nacional

existe un gran número de publicaciones de grupos de expertos asociaciones confederaciones de salud mental que han estudiado los efectos que ha provocado la pandemia sobre la salud mental y el estado

algunas de ellas pivotan en torno a sectores poblacionales concretos como puede ser la infancia la adolescencia personas mayores vulnerables y mujeres otras en torno a variables sociodemográficas ambientales ocupacionales

donde estos estudios se realicen las conclusiones son coincidentes por tanto consideramos que en este aspecto de conocimiento de la realidad de las consecuencias a nivel psicológico hay ya un importante trabajo realizado que arroja conclusiones coincidentes y que quizá debería hacernos reflexionar

un nuevo estudio concreto es más sensato aprovechar la abundante bibliografía y trabajos con los que ya contamos y sus conclusiones por ejemplo desde la upv ehu y en colaboración con la uned

con la universidad de murcia y con la universidad miguel hernández se ha presentado un informe de investigación denominado las consecuencias ecológicas de la covid diecinueve y el confinamiento

la investigación con exploración cualitativa y cuantitativa establece conclusiones y recomendaciones que son plausibles

por tanto nosotros creemos que el impacto de la pandemia en la salud mental y emocional de la sociedad está ya muy determinado y analizado en todos esos trabajos y que aprovechándolos lo importante

se mantengan especialmente vigilantes ante estas consecuencias emocionales y sobre la salud mental garantizando la atención por la red de salud mental cuando así se requiera y que para todo ello cuenten con la experiencia y conocimientos de los profesionales personas expertas agentes y asociaciones que desarrollan su labor en el ámbito de la salud mental en la cav

en nuestra enmienda como saben porque ha sido trasladado a esta cámara a través de la documentación que durante estos meses nos ha remitido al departamento de salud esta ha sido una preocupación

desde marzo de dos mil veinte se puso en marcha un programa específico de primera atención telefónica y telemática por eventos emocionales relacionados con la crisis del covid

y que también permite la eventual remisión a la atención primaria o a salud mental cuando se considera necesaria

en osasun eskola y en el caso de las redes de salud mental y servicios hospitalarios ha habido refuerzos puntuales y un planteamiento a futuro de crecimiento en recursos hospitales de día aumento de camas de hospitalización relacionados habitualmente con las áreas en las que se han experimentado un aumento en la casuística como la mencionada de salud

a esta cámara se nos preguntaba cómo nos preparamos el presupuesto destinado

se incrementó en cinco y casi diez millónes de euros respectivamente si los comparamos con el año prepandémico de dos mil diecinueve para finalizar creo que es importante lanzar un mensaje a nuestra ciudadanía

están especialmente vigilantes ante las consecuencias emocionales y particularmente sobre los efectos que la pandemia haya podido dejar en relación con la salud mental y con ellos otros ámbitos institucionales también se suman a esta preocupación como portugalete ermua muy recientemente el ayuntamiento de bilbao que han puesto en marcha

que ofrecemos desde las instituciones vascas en eso es en lo que estamos centrados porque somos conscientes de esa necesidad nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

el estrés al que hemos estado sometidos por las situaciones de confinamiento

y en los casos más extremos pérdidas de seres queridos

en los colectivos más vulnerables niños niñas adolescentes y personas mayores se ha constatado y sobre todo en el ámbito infanto juvenil un aumento de la casuística de los casos de gravedad moderada y elevada más ingresos más consultas y más urgencias

y ahí es donde el departamento de salud debe seguir poniendo especial atención y de ahí

egiten dira adibidez la más precisa la encuesta de salud que se realiza de forma sistemática en periodos de tiempo determinados por lo tanto los datos objetivos

análisis del consejo asesor de salud mental en áreas como la psiquiatría de niños y adolescentes

la prevención de la conducta suicida el estigma y la salud mental y un largo etcétera en estos análisis del consejo asesor de salud mental como se puede observar

con la radiografía que se obtiene de todos estos análisis el departamento no se ha quedado de brazos cruzados ha actuado por ejemplo aumentando las inversiones en salud mental infanto juvenil abriendo hospitales de día y desarrollando la estrategia de prevención del suicidio les recomiendo la lectura de todos estos estudios porque si los revisaran y a mí me ha ocurrido porque yo no soy experta en esta materia

quieren lo que ya tenemos pero con una matización quieren que nosotros los grupos entremos también en un campo el de la salud mental del que casi ninguno es conocedor

expertos agentes y asociaciones que actúan en el ámbito de la salud mental

son ustedes señora garde me dice a mí que mantenemos una línea roja son ustedes quienes os marcado una línea roja inamovible

plantear ahora una actuación extraordinaria para el diagnóstico de la salud mental de la sociedad no va a aportar elementos novedosos respecto a lo que ya se tiene en estos momentos

cuando además hoy ya nos han expuesto los resultados de dicho diagnóstico cuando ya nos indican que está deteriorado

previamente propuestas y conclusiones eso sí sin perjuicio de ello sí veamos necesario dedicar una especial atención a la salud mental aunque la señora garrido

revolucionario sea pedir un diagnóstico pero bueno nosotros hemos presentado una enmienda en la que vemos necesario dedicar una especial atención a la salud mental dada la relevancia que le damos

en línea con las necesidades que se pueden comprobar de todos los informes análisis y estudios citados pero eso sí sin mezclar conceptos y sin alarmismos

en primavera del dos mil veinte ciertos expertos introdujeron la idea de una segunda ola de repercusiones emocionales y psicológicas

en invierno pasó a ser la cuarta y así sucesivamente pero la realidad es que en dos mil veinte

poner un ejemplo la de bizkaia registró una reducción del veinte por ciento en sus primeras consultas

pero este año con consultas presenciales en los centros de salud mental el número de nuevos pacientes extrapolando los datos a abril serían por debajo de los de años anteriores dos mil quinientos más o menos

y el problema no es la ola de malestar y fatiga pandémicas sino saber detectar a tiempo los nuevos pacientes graves la atención y los recursos que se destinan a salud mental siempre pueden ser reforzados está claro y ese es el ánimo de este gobierno prestar un servicio cada vez mejor pero los datos también nos dicen que euskadi figura entre las comunidades mejor dotadas con más de mil quinientos profesionales en la red salud mental

y con esta situación los servicios de salud mental hospitalarios y comunitarios a excepción hecha de la casuística infanto juvenil que ya he comentado yo antes ha funcionado con normalidad

con lo que sí osakidetza está atendiendo adecuadamente la salud mental no menos llamativo es el alegato de algún grupo parlamentario que reclama mejorar los servicios de salud mental relacionando la covid con una elevada tasa de suicidio

no hay aun datos que permitan establecer tal asociación de hecho con los datos que sí tenemos de enero a mayo de dos mil veintiuno y extrapolándolos a todo el año el número de suicidios este dos mil veintiuno

también se indica que gran parte de la ciudadanía ha tenido síntomas de ansiedad o depresión desde el inicio de la crisis el temor el hastío la preocupación el desánimo son reacciones humanas normales en una situación anómala que se está prolongando y que lleva para algunas la muerte de seres queridos la pérdida de trabajo y la inseguridad laboral pero no son enfermizas

por las condiciones socioeconómicas derivadas de una crisis imprevisible es cuanto menos cuestionable

tenemos mecanismos para evitar que esa situación afecte de manera importante a nuestra salud

y otro peligro dedicar recursos a esas presuntas necesidades supone detraerlos de los dedicados a personas con trastornos

que no tengo conocimiento en la materia lo dicen dos psiquiatras de la red de salud mental de bizkaia

en esta época incierta la responsabilidad es la de dar una respuesta adecuada a las necesidades reales con todos los recursos programas

que expondré en mi segunda intervención pero en ningún modo amenazar reiteradamente con epidemias de sufrimiento que terminen

gracias señora presidenta muy brevemente voy a utilizar este tiempo para explicar

la pandemia y la gestión que se ha hecho de ella han sido caldo de cultivo de problemas

y no estoy hablando solo de enfermedades sino también de patología previa que debería de centrar buena parte de los esfuerzos del gobierno vasco y de la administración sanitaria pronto nos vamos a enfrentar a problemas que hoy están latentes que aún no se han manifestado soledad miedo desconfianza estrés ansiedad por no hablar del drama de miles y miles de personas

a familiares muy cercanos que no han podido siquiera despedirse de ellos y no debemos olvidar también a quienes vivían de algo y ahora apenas pueden vivir muchas miles de personas que han tenido que renunciar a su proyecto empresarial

que no saben cómo van a superar este bache toda su familia todo esto va a pasar factura no cabe duda y prevenirlo

no se trata tanto de disponer de más camas para enfermos mentales o de cifrar el alcance de la enfermedad mental en nuestra región hace falta más confianza y más claridad en los mensajes necesitamos confiar en el futuro dejar de temernos unos a otros necesitamos recuperar optimismo abrir nuestro negocio con garantías y levantarnos cada mañana con ganas de vivir el día este gobierno debería empeñarse en que así sea primero atención a los problemas mentales que ya se han manifestado evidentemente pero después mucha prevención para que quienes rondan la enfermedad mental

y si sucede más recursos por supuesto para atenderles pero no olvidemos que lo más importante es la prevención y es lo que más necesario creemos en estos momentos muchas gracias

eta abar hemos hablando de infinidad de cosas

que abordamos desde la perspectiva de la salud emocional y mental de la ciudadanía de todas nosotras porque no me cansaré de decirlo nos ha tocado a todas aunque bueno parece que aquí estáis superfuertes

no es así y sin hacer dramas que yo no he hablado de olas

y es la primera vez que lo debatimos y no es casualidad es parte del silencio histórico y sistemático que envuelve a la salud mental es parte del estigma y del tabú

la salud emocional y mental y esto solo para empezar eh para abrir un poco el melón que es así de gordo en cuanto a la salud mental para fijar unas bases mínimas y cosas que son un poco incuestionables y ese era mi intención nuestra intención con esta iniciativa y lo hemos hecho

sosegado el debate intentando llegar a acuerdos eta begiratu zer topatu dugun bueno y de cara a otros retos que también vienen no solo responder al impacto

la renovación de la estrategia y los planes de salud mental los propios presupuestos a ver si en esto nos dejan participar porque vamos está difícil porque como ya

genial y relacionado con esto pues para responder a todo ello para nosotros importante saber en qué situación nos encontramos porque igual el departamento de salud tiene todos los datos pero el resto no los tenemos

no nos esperábamos ha tenido un impacto grave que no nos imaginábamos pero no le estoy diciendo yo o sea lo que ha pasado con los servicios infanto juveniles grave y está ahí y yo no me lo

vamos a darle el sitio y el análisis sosegado y exhaustivo que pedía pero bueno

a raíz de la intervención de la señora berrojalbiz he estado revisando

se me ha olvidado la leí en su momento para hacer la enmienda y digo

el pnv esa especie de agresión a lo que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno y la verdad es que he leído la justificación y creo que hace una descripción

de crítica muy leves por lo que yo acabo

de falta de seguridad en trabajadores que sobre todo además en un primer momento ya hemos discutido en este parlamento

que ha explicado bueno ellos no están de acuerdo con que haya que hacer un diagnóstico específico ha explicado las razones ha explicado lo que se hace etcétera pero el partido nacionalista vasco pues le veo que ha necesitado

como esta la verdad es que no lo entiendo miren yo puedo entender ustedes nos dicen ya se hacen encuestas

concreto que además puede perfectamente tener en cuenta todos esos estudios como

para el impacto de la pandemia en la salud mental que es lo que se proponía y que no quiere decir que osakidetza no esté haciendo nada en relación a la pandemia en la salud mental pero un diagnóstico concreto y con él

aquí se proponía y tal vez si se hubiera negociado también puede ser verdad que podía haberse llegado a un acuerdo de diagnóstico concreto y en su caso un plan concreto si de ese diagnóstico

de un plan concreto porque nosotros creo que con esta transacción con esta propuesta no estamos haciendo

como se nos decía hemos dado algunos datos generales que son conocidos

obviamente lo tendrán que hacer lo tendrán que dirigir las y los profesionales en este caso

que ya hacemos nosotros el diagnóstico pero también se nos ha preguntado o de alguna manera se nos ha exigido qué tipo de diagnóstico nos proponen entonces

o solamente estamos pidiendo un diagnóstico yo creo que solamente estamos pidiendo un diagnóstico específico porque pensamos que la situación lo requiere y luego hay una cosa que me llama la atención porque ha salido muchas veces

y que en una parte yo estoy de acuerdo y he dado la razón muchas veces cuando se nos ha dicho en eso de usted ha dicho zapatero a sus zapatos dejen a los expertos bueno esto es una iniciativa política esto es una iniciativa

y de hacer un plan hay expertos usted los ha citado a dos psiquiatras si no recuerdo mal y hay otros expertos me imagino que la señora garde cuando trae esta iniciativa también lo han hablado con expertos no creo que se le haya ocurrido a la señora garde un buen día

hacer eso y desde luego a mí cuando hago una enmienda de este tipo cuando he hecho esta enmienda

ya le digo a usted o a ustedes que no estoy ahí arriba sentado y digo bueno voy a ver qué pongo

que lógicamente sabe hay muchos que nos están diciendo claro que sí sería bueno

y gente que son trabajadores de osakidetza y no

que los que ustedes consultan pero ante esto no se puede decir zapatero a

porque se está proponiendo un diagnóstico simplemente un diagnóstico y por lo tanto yo creo que con eso tenemos que tener cuidado porque si no este parlamento pues casi no podríamos hablar de nada podríamos hablar de declaraciones muy generales a las que muchas veces también se nos dice para qué traen aquí ustedes declaraciones tan generales después creo que vamos a hablar

de una y con el tema simplemente mencionar con el tema de la reducción de consultas yo en alguna otra ocasión con otro tema también de salud

porque es una de las cosas que también se van a tener que analizar y que también nos dicen los famosos expertos la reducción de consultas no quiere decir

y en salud en general hay que analizar también por qué por qué durante la pandemia

está acudiendo menos a determinadas consultas

permiso de la presidencia lo voy a hacer desde el escaño bueno yo simplemente creo que no puedo entender que no sea compartido

que tenemos del impacto en la salud mental y emocional de las personas y especialmente las más vulnerables la situación de la pandemia por eso yo creo señora berrojalbiz que en este sentido

el respeto y me ha parecido ver en su intervención demasiada autocomplacencia y ya se hacen estudios si los conocemos claro es que hay órganos específicos del gobierno vasco faltaría más que con el montante de millónes

no se hagan estudios sobre temas que conciernen y temas importantes a la ciudadanía vasca pero es que no estamos hablando de eso estamos hablando

que ha adquirido una relevancia especial a raíz de la pandemia y como digo con incidencia en la salud mental de las personas con episodios concretos

aparecido y que merecen una atención especial y en ese sentido yo creo que no nos podemos conformar o adoptar una actitud conformista con los estudios que se puedan hacer

merece un tratamiento específico que tengamos ese diagnóstico esa radiografía de cuál es la situación y especialmente de personas y colectivos muy vulnerables me estoy acordando de las personas mayores en las residencias me estoy acordando de la gente que vive sola a esas personas no les podemos responder con estadísticas o unos estudios

especial con la situación que han vivido por lo tanto lo que le vuelvo a decir creo que su enmienda podría haber sido más ambiciosa y si no ha sido así haber buscado un punto de encuentro

que vaya más allá de su enmienda con el resto de los grupos que oportunidad tenía habiendo visto los planteamientos que teníamos el resto de grupos en nuestras enmiendas de totalidad besterik gabe eskerrik asko

gracias señora presidenta yo

nos importa a todos y a todas y yo no voy aquí a competir a ver a quién le importa más a quién le importa menos

pero nosotros hemos hablado de la salud mental cuando se presentó por ejemplo la estrategia del propio departamento y se dedica toda una parte a salud mental

al año prepandémico de dos mil diecinueve en salud mental y

con personas que se preocupan por estas cuestiones e incluso hemos participado yo recuerdo una participación con laura garrido estuvimos en el foro

los diferentes grupos que fuimos invitados por esa asociación y por ese foro y también recibimos por supuesto la información de tantos y tantas profesionales de osakidetza que se dedican

a este ámbito yo le decía que no voy a competir

le interesa esto y hoy esta iniciativa que trae

es que esta iniciativa eh bildu la ha llevado a los ayuntamientos de euskadi y en cada ayuntamiento ha pedido que se haga un diagnóstico

no me parece serio la última vez en el pleno de mayo del ayuntamiento de bilbao donde por cierto se pactó una enmienda propuesta

que fue lo que finalmente se aprobó y es establecer ese proyecto piloto del que les he hablado en mi primera intervención por lo tanto yo le digo señora garde no voy a competir

pero por pedir a cada institución que haga un mismo diagnóstico

como planteamiento general diría que en la iniciativa se hace una lectura que puede ser

a las conclusiones a las que se llega un diagnóstico pero de qué tipo de qué discrepa de los análisis e informes encuestas que hemos citado tanto el señor rico como yo

de qué expertos se habla distintos de los que ya se cuenta asociaciones agentes expertos profesionales

en su réplica a nadie le he visto contrargumentar

lo único que he visto es críticas por no aceptar su diagnóstico abierto es lo único que sabemos el señor rico y yo del diagnóstico que piden es evidente

pero ya lo he dicho es evidente el impacto que ha tenido la pandemia en nuestras vidas la capacidad adaptativa de la sociedad ha sido elevada también y la respuesta que están dando los poderes públicos constante aunque como ya he citado

sí señora garrido quién ha dicho que no haya que mejorar les he dicho que no hay necesidad de hacer el diagnóstico como el que plantean y yo he dado datos cifras para contrarrestar sus afirmaciones yo no he escuchado ningún dato a ese respecto señor

me gustaría indicar porque no lo he dicho en mi primera intervención ese trabajo que están haciendo constante los poderes públicos en este caso el departamento de salud

de mejora me gustaría mencionar el plan de apoyo emocional a pacientes familiares y profesionales

personas programa que por cierto para quienes reclaman informes también cuenta con su correspondiente informe y estudio otra de las herramientas puestas en marcha por osakidetza para toda la ciudadanía es la habilitación de la web del departamento a través de osasun eskola con información y sencillos consejos para el manejo

y el ocho por ciento han completado el test de autoevaluación de su carga emocional proyectos muy útiles teniendo en cuenta los objetivos señalados por osasun eskola y más el programa betirako de atención al duelo para personas que han perdido a seres queridos por el covid

como consecuencia de la pandemia y todo ello acompasado de una mayor dotación presupuestaria

que el presupuesto se ha reducido en temas de salud mental pues el importe del contrato programa y conciertos aumenta de ciento ochenta y cinco a ciento ochenta y nueve millónes mayores inversiones en salud mental uno coma cuatro millónes que suponen un dos por ciento de todas las inversiones frente al cero coma cuarenta y siete por ciento que supusieron en dos mil veinte el capítulo de transferencias subvenciones y gastos corrientes

hay ciertas partidas como la atención socio sanitaria que suben un sesenta y tres coma cinco por ciento y que recoge el incremento del convenio de trastorno mental grave con la diputación foral

y visto lo anterior y visto las réplicas me preocupa el catastrofismo y la comparación sesgada de los datos parciales y puntuales porque ustedes saben que la salud mental y emocional es algo que preocupa y ocupa a este grupo parlamentario y al

y es una prioridad del departamento de salud y no como el otro día lo definía en el pasado pleno de control la señora gorrotxategi como una cuestión subsidiaria sino como una tarea principal la salud mental y emocional

muy compleja en la que los técnicos y los expertos están continuamente trabajando están en constante observación y estudio dotados de un elevado número de profesionales

están protegiendo no solo sus derechos y sus empleos sino los derechos y los empleos

porque están demostrando que no se puede actuar impunemente en contra de ese empleo y en contra de esos derechos por eso han desatado la ola de solidaridad que han desatado

para todo este país y además no solo están trabajando o recibiendo solidaridad

con muchísima generosidad están distribuyendo esa solidaridad allá donde haya un conflicto eskerrik asko benetan

está aprovechando por un lado la coyuntura negativa y el parón de actividad generado por la crisis de la covid y por otro lado las necesidades indudables

para renegociar a la baja o para deteriorar las condiciones laborales de su plantilla y para deshacerse de trabajadores y trabajadoras con antigüedades y derechos y en su caso sustituirlos más adelante precarizada creemos que la dirección de tubacex está afrontando este conflicto como una especie de segunda vuelta

en el cual en un escenario también similar con la perspectiva de la transición energética y

se llegó a un acuerdo en el cual la empresa consideraba que estaba en condiciones de mejorar las condiciones de la plantilla las perspectivas no eran muy diferentes a las de ahora en términos de transición del sector del oil gas pero en dos mil dieciocho

y da la impresión de que en estos momentos la empresa lo que está tratando de hacer es aprovechar como suelo decir que la covid pasa por valladolid

para imponer políticas de limpieza y políticas de retroceso

y las trabajadoras creemos que la empresa tiene entre ceja y ceja y así lo deducimos de los informes que hace que publica en su página web y que manda a los medios de comunicación tiene entre ceja y ceja que las condiciones laborales de esta plantilla o de estas plantillas de las fábricas

y que eso es intolerable no tanto porque se ponga en peligro la viabilidad de la empresa al contrario estas plantas son los auténticos no solo matrices y cunas de todo el grupo tubacex sino que son los auténticos motores en la actualidad por tanto decía que no se quiere deteriorar tanto

sino porque desde un punto de vista ideológico se considera que son una especie de privilegiados langileek epaitegietara eraman dute erea

nahi dituzte hay un problema hay un problema para la empresa en este caso que la legislación del estado español se modificó

para precisamente y de forma específica prohibir los despidos por causas motivadas con la coyuntura económica generada por la covid hemeretzi esto se hizo a través en un primer momento

específicamente no considera como válidas como razones justificativas de despidos aquellas que sean consideradas como generadas por la covid hemeretzi y esto está como decía en los tribunales

estudiado en su momento en la carrera que él entendía por derecho las profecías acerca de lo que los tribunales harán realmente ni más ni menos

de confiar en que los tribunales que han tenido esta misma semana los juicios de las plantas de amurrio y de laudio vayan a actuar

esperemos que así sea y como decíamos hay una sólida base jurídica precisamente hecha ex profeso para evitar este tipo de situaciones que ampararía una sentencia favorable a los trabajadores como se dio por ejemplo en el caso de itp pcb

los despidos pero no me lo quiero jugar todo a esa carta como decía no soy profeta y no puedo profetizar lo que

los jueces en este caso particular en todo caso sí queremos decir que políticamente nosotros no hacemos aquí

en otros foros que no nos corresponden pero aquí como marco del debate político creemos que es importante establecer que una mayoría de esta cámara dé a los trabajadores y trabajadoras su respaldo y que comparta su argumentación

son causas coyunturales y que por tanto los despidos no tienen razón de ser argi dago gaur aprobatuko da zerbait

aurkeztu dute zuzenketa bat que busca en alguna medida nadar y guardar la ropa de todas formas quiero anunciar que nuestro grupo

mantendrá la propuesta original porque creemos que explicita las cosas que tienen que ser explicitadas fundamentalmente

la retirada del ere y la readmisión de las personas despedidas

de la moción que presentan los partidos que respaldan al gobierno porque entendemos que contiene algún elemento interesante

enmienda que es literalmente un corta pega de la que se presentó en el ámbito de la aeronáutica tan corta pega que es que sigue hablando de las empresas en plural

en singular y en ese momento el grupo de elkarrekin podemos votó favorablemente de hecho fue firmante de esa transacción

zuzenketa honekin incluso hay problemas en la propia fórmula que se remite a la negociación colectiva es decir no se atreven a explicitar un rechazo al erte

y como aquí decía que no somos un tribunal sino que somos un órgano político me gustaría recordar una cuestión en referencia precisamente al papel de la negociación colectiva he hecho antes mención a una sentencia a la del caso itp pcb en la que se declaraba la nulidad

del ere y por tanto la obligatoriedad la readmisión de los trabajadores y trabajadoras despedidas en esa sentencia

de forma extensa como no puede ser de otra manera la nueva legislación introducida por el gobierno para evitar precisamente que al calor de la crisis de la covid se produjeran despidos masivos

se decía que la voluntad de las partes expresada en la negociación colectiva está en cierta forma criogenizada puede ser un poco pomposo la forma de expresarlo

hacía una expresión clara de voluntad para prohibir determinados despidos en determinados contextos y que eso de alguna forma restringía

que existe en la negociación colectiva para determinar según qué cosas y por tanto proscribía de forma expresa la posibilidad de que se utilizara la coyuntura generada por la covid para realizar despidos

está en un momento de dificultades y además son dificultades como decía doblemente motivadas tanto por la coyuntura de la covid como por la transición energética que

ya hemos comenzado pero esa transición tiene que ser una transición justa

transición y justa y perdón por la perogrullada transición significa que es un proceso que

de los sectores que están hoy ligados a esa transición o que van a tener a esas energías fósiles que van a tener que ir perdiendo peso de forma progresiva

porque evidentemente quienes paguen el coste de esta transición no pueden ser los sectores trabajadores ni las comarcas como en este caso la comarca de aiaraldea que tienen una fuerte dependencia de sectores ligados oil gas

en relación a la actividad de la empresa tubacex como es la mejora global de la actividad económica el fuerte repunte que estamos viviendo en los últimos tiempos del precio del petróleo

el levantamiento de las sanciones a irán o el acuerdo arancelario con estados unidos que ponía ciertas barreras por parte de estadounidenses a las importaciones de productos de acero vascos en este caso por tanto estas mejoras coyunturales este repunte

a la que teníamos en el año pasado cuando la empresa pone en marcha este plan de reducción de la plantilla lo que nos da es oxígeno no evita la necesidad perentoria de que esta y como el resto de empresas del sector acometan un proceso de transición

con las exigencias de la transición energética pero si nos da tiempo eta hori da eskatzen duguna eskatzen duguna langileak

en tubacex no sobra nadie eskerrik asko casanova jauna

una vez más el apoyo y la solidaridad de parte de la coalición elkarrekin podemos izquierda unida con las y los cientos de trabajadores de tubacex que llevan más de

indefinida y por lo tanto hace cuatro meses sin salario que se dice pronto

defender a sus compañeras y compañeros formalmente despedidos y despedidas en estos momentos un sacrificio que están realizando no solo en defensa del empleo y las condiciones laborales en nuestra opinión

como acto de solidaridad de quienes no han sido despedidos con sus compañeras y compañeros desahuciados por la empresa un ejemplo para muchas y muchos lo estamos viendo en esas movilizaciones conjuntas en esas dinámicas conjuntas de diferentes empresas ejemplo para muchas

un ejemplo para nuestro grupo parlamentario un ejemplo que no se debe olvidar y un ejemplo del que este parlamento

buena nota o debe tomar buena nota una manera de hacerlo podría ser aprobando una iniciativa que las y los propios trabajadores nos han pedido que traigamos a este parlamento y que además nos habían pedido que firmemos

un cribado de preferencias esa es para nosotros una primera razón con el suficiente peso para defender sin ningún tipo de titubeo la proposición no de ley y para haberla mantenido a pesar de lo que ha explicado el señor casanova

para algo que nos parece muy importante estar del lado de las y los trabajadores pero sobre todo estar con las y los trabajadores aquí

entre otras cosas además de por solidaridad de clase desde luego yo soy clase trabajadora pero también porque estamos convencidas de que les asiste la razón en esto que están reclamando la historia la conocemos todas

en junio de dos mil veinte la empresa deja caer que precisa realizar un ajuste salarial por valor de diez millónes de euros un ajuste que equivale al despido de ciento cincuenta personas en las plantas de amurrio

doscientos empleos eventuales que ya dejaron de prorrogarse anteriormente cerca de doscientos personas que ya habían quedado

para plantear un despido colectivo era que la crisis que está sufriendo el sector

estaban mermando enormemente las perspectivas de la empresa

el directivo de la empresa jesús esmoris declaraba que la empresa tenía ciento setenta millónes de euros en caja indicando además que a pesar de la incidencia del coronavirus

nos parecen contrarios contradictorios en paralelo ese mismo año dos mil veinte tubacex

que frena la actividad extractiva pérdidas coyunturales porque en dos mil diecinueve la empresa cerró con un beneficio de más de once millónes de euros un resultado fruto de explotación de sesenta y siete millónes de euros en dos mil dieciocho el año anterior

y además récord absoluto de beneficios por eso cuando nuestra coalición también trajo en el mes yo creo

se pronunciase en contra de despidos colectivos en aquellas importantes empresas que han tenido beneficios millónarios durante años lo hacíamos

porque nos parece un auténtico despropósito que esto ocurra y pensamos que esto es también lo que está ocurriendo de alguna manera en tubacex una empresa que ha tenido importantísimos beneficios que sigue estando en clara expansión a pesar de que pueda tener unas dificultades concretas en un momento

y que sin embargo decide despedir decenas de trabajadoras y trabajadores que además están planteando alternativas a estas medidas que solemos llamar traumáticas tubacex no tiene ningún problema de viabilidad

ninguno no tenía ni tiene ningún problema de continuidad como empresa si no hubiera recurrido si no recurre a estos despidos

pero hay una diferencia para nosotros muy importante

supongo a los propietarios a los accionistas de la empresa se trata de la rentabilidad de los capitalistas a costa de la desgracia lo voy a tildar desde luego de desgracia de las y los trabajadores que han levantado además esa empresa con su esfuerzo

tubacex como hemos dicho ha tenido beneficios millónarios hasta entrado el año dos mil veinte y mantiene ese remanente de caja que mencionaba y también como he dicho hemos escuchado a sus directivos

en foros empresariales donde les interesa hablar de esta manera y ante accionistas de buenas expectativas a medio plazo por lo tanto

de ciento cincuenta personas en este momento ciento veintiocho ejecutadas además el grupo tubacex en los últimos años ha comprado varias empresas

clara y lo ha hecho además en muchos casos con prestamos públicos ha llegado a acuerdos con aliados saudíes para expandirse en oriente medio a la vez pretenden vendernos que les es absolutamente necesario despedir a estas ciento veintiocho personas en euskadi pues nosotros desde luego no comulgamos con ruedas de molino y a la vista está que las y los trabajadores tampoco comulgan con ruedas de molino

tampoco lo hiciera según la empresa estos despidos están pensados para paliar problemas estructurales que sufre debido

los productos petróleo y gas pero a la vez la misma dirección de la empresa dice que

diversificación de productos se estaba haciendo de manera correcta antes de la pandemia y presentaba buenas perspectivas de futuro nosotros nos preguntamos con qué se tienen que quedar los trabajadores porque son mensajes contradictorios con qué se tienen que quedar las instituciones que han aportado económicos de alguna u otra manera al grupo empresarial nosotros pensamos que a estas alturas ha quedado demostrado que lo que se pretende es destruir empleos de cierta calidad que puedan ser sustituidos en el futuro por empleos más baratos y con otro tipo de condiciones por la empresa directos o indirectos

más precarios pensamos que ese es el objetivo un cambio de modelo en la empresa apostando por otro tipo de empleos más precarios y servicios

que no es una necesidad que es una apuesta empresarial claramente intencionada el comité de empresa que hoy una vez más está aquí con nosotros

y también sus razones para exigir a la empresa que se retire ese planteamiento de expediente de regulación que se retiren los despidos para así sentarse a negociar que se retiren los despidos para así sentarse a negociar

no ha estado dispuesta a discutirlo en ningún momento su único empeño ha sido despedir la dirección de la empresa también ha pasado por este parlamento en una ocasión

cien despidos que en ese momento estaban ya ejecutando vinieron a la ponencia de aiaraldea como saben ustedes a hablar de la reactivación económica de la comarca un asunto muy importante pero no vinieron a hablar de esto ya nos lo recordó la presidenta de la comisión que venían a hablar de la reactivación de aiaraldea no fuera que algún parlamentario se desviase un poco del tema y hablase de los despidos bueno obviamente yo me desvié del tema en un momento concreto no podía ser de otra forma

al directivo que se replantease esa desacertada decisión de despidos

a esta cuestión concreta desde luego no se molestó en responder supongo que algo parecido es lo que se han encontrado los trabajadores cada vez

ese planteamiento y ahora los trabajadores nos están pidiendo porque son ellos los que han venido a este parlamento nos están pidiendo a los grupos políticos que demos

solicitando a la empresa de manera expresa como parlamento que retire ese expediente readmitan a todas las personas despedidas y luego sí sentarse

para que la firmásemos todos los grupos que quisiéramos y yo hubiera estado encantado de que

más y que hoy no tuviéramos dos iniciativas una enfrente de la otra y la verdad es que esta semana que hemos estado siguiendo

importante porque hasta los jueces les han planteado a la empresa esta misma semana

y por lo tanto de los despidos para sentarse a negociar en un proceso de conciliación laboral es decir

los trabajadores hasta los jueces lo han propuesto y la empresa ha dicho que no por lo tanto para nosotros

no está dispuesta a negociar nada solo quieren los despidos antes de que llegue la reforma laboral anunciada

no podemos apostar todo a esto aunque desde luego los juicios están ahí y deseamos

pero hoy nos toca a nosotros mostrar nuestro apoyo firme y pensamos

de hacerlo es aprobando la iniciativa que nos traen las propias trabajadoras y trabajadores porque es verdad que hay otras fórmulas y yo sé que los grupos que apoyan al gobierno me van a hablar de su propuesta de la enmienda a la totalidad que han presentado que nosotros no nos vamos a oponer a ella pero la iniciativa que traen los trabajadores

dice expresamente a la empresa retiren el ere readmitan a los trabajadores es el mensaje claro y directo creo que el parlamento muchas veces ha defendido este tipo de posiciones no debe tener miedo a dirigirse en ocasiones concretas y era la patronal o bien en este caso una empresa concreta

esto como parlamento no nos gusta y le pedimos que lo transforme como a veces como parlamento nos dirigimos

a otros sectores pensamos que esa es la mejor forma sobre todo cuando hemos visto y hemos comprobado que no hay una voluntad de diálogo o de negociación por parte de la empresa

nosotros creemos que ese es el mejor mensaje decirles hoy aquí señores directivos de tubacex retiren el expediente de regulación de empleo y procedan a la readmisión de las personas de las mujeres

esto es lo que plantea la proposición no de ley esto es lo que esperan las y los trabajadores guk oso argi daukagu langileekin gaude

empleo y trabajo como en privado hemos tenido la oportunidad de trasladar en diversas ocasiones nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de tubacex

solidaridad y apoyo que antes de seguir y hoy les quiero reiterar también aquí desde esta tal y como lo hemos hecho siempre los socialistas desde todas las instituciones nosotros siempre hemos trasladado que la pérdida de empleo siempre es la peor noticia

siempre tienen que agotarse las vías de diálogo es algo que a nosotros nos parece esencial fundamentalmente para evitar situaciones tan traumáticas como a las que hoy se están enfrentando incluso hemos dicho públicamente y hoy reiteramos que quienes no ejerciten esas vías de diálogo con esa buena fe

reproche por nuestra parte en este caso concreto es evidente que las vías de diálogo no han dado los resultados esperados porque en estos momentos estamos en un proceso judicial que está pendiente también somos muy conscientes del reto del sector como también lo somos de primera mano del reto que afronta la comarca de aiaraldea y que se está trabajando también en la ponencia constituida al efecto en este parlamento y precisamente por eso

seguir incidiendo en el valor de las vías de diálogo con el objetivo principal de conseguir acuerdos y conseguir evitar situaciones traumáticas como las que hoy

y en ese sentido cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar a los trabajadores y trabajadoras tanto en la comisión como en las reuniones privadas que hemos mantenido con ellos

porque a través de la negociación colectiva y el acuerdo las empresas y los representantes legales de las personas trabajadoras busquen soluciones

que permitan también a las empresas afrontar las dificultades que puedan estar sufriendo y en cada ocasión tanto en público como en privado siempre ha habido un ofrecimiento concreto el de la vía de la mediación pero como saben esta mediación institucional solo es posible si ambas partes lo solicitan y desgraciadamente eso no ha sido así en este proceso el departamento de trabajo y empleo ha mantenido contactos tanto con la empresa como con los representantes de las personas trabajadoras

con el fin de que garantizando y respetando la voluntad de las partes en la negociación

y que impidiera despidos sin embargo al final esa mediación o facilitación no se acabó

hoy tenemos como he dicho al principio un buen número de personas que han perdido su empleo y procedimientos judicializados ante un escenario de incertidumbre y nosotros ante esta situación

del mantenimiento de los puestos de trabajo y esa es nuestra postura y ese es nuestro objetivo pero en este o en cualquier otro proceso de sectores en crisis que estamos viviendo porque la industria tubular representa para álava y para euskadi también un sector importante

de la crisis del dos mil ocho y ahora está muy condicionada por la transición energético ambiental pero también al igual que otros sectores

y en este parlamento hace bastante poco pudimos hablar concretamente también del sector aeronáutico y de la situación de crisis que está viviendo

presentado es una copia literal de la enmienda transaccional

lo cierto es que el camino para todos esos conflictos a nuestro juicio debe ser el mismo

para evitar situaciones traumáticas y conseguir el fin último del mantenimiento del empleo y eso es lo que recogemos en nuestra enmienda nosotros compartimos que con carácter general

acomodar al sector de forma resiliente mantener y aprovechar el conocimiento específico de las y los trabajadores y la adaptación a los nuevos retos que afronta el sector y esto es necesario si nuestro objetivo principal

y evitar la precarización de las condiciones laborales y en este sentido en relación a tubacex instamos a que a través de la negociación colectiva y el acuerdo

busquen soluciones alternativas a esos despidos que permitan a las empresas afrontar las dificultades que están sufriendo considerando fórmulas coyunturales que eviten despidos posibiliten la readmisión de las personas despedidas y en ese mismo sentido instar al gobierno vasco a continuar con ese ofrecimiento que siempre ha existido y con ello a colaborar activamente para que se mantengan abiertas esas vías de diálogo

es absolutamente necesario y conscientes de los muchos retos que vive el sector instamos también al gobierno vasco a seguir trabajando en colaboración y coordinación con el conjunto del sector y con el resto de administraciones públicas a fin de adoptar las decisiones oportunas que permitan a la industria tubular asumir los retos de consolidación competitividad

hemos podido conocer de primera mano los planteamientos de los representantes de las y los trabajadores y también de la empresa atendiendo a todo ello hemos presentado un texto que entendemos que responde con coherencia a la situación que hoy se nos plantea

no solamente en este debate sino en otros de las mismas características y en algunas otras declaraciones una vez desbrozado ese planteamiento el planteamiento más superficial

se basa fundamentalmente habitualmente en dos argumentos

el gobierno este gobierno se pone de perfil en esta cuestión hoy si bien es cierto que esta segunda cuestión prácticamente la ha obviado

no va a ser para nadie una sorpresa que yo diga que no comparto en absoluto

no estar de acuerdo con el análisis que usted hace y además además de esos dos elementos existen otros elementos importantísimos en este debate

fundamentalmente dos lo coyuntural y lo estructural cada vez que nos encontramos en un debate como este su primer argumento es esto es una situación coyuntural por lo que hay que aplicar medidas coyunturales qué es lo coyuntural

hacer alusión a una situación concreta conforme a esa definición podríamos estar cerca pero también puede referirse a una dimensión temporal y también y también puede referirse a una situación compleja debido al número de elementos que están involucrados sí la coyuntura como una articulación de elementos e incluso etimológicamente la palabra del latín coyuntura

en esta lógica la coyuntura se presenta como la conjunción de circunstancias de las cuales depende el éxito de una actividad de una empresa o de un sector lo coyuntural

el totalmente coyuntural y por tanto también al señor hernández y por tanto no debemos preocuparnos por ningún otro elemento nosotros consideramos que no es solo coyuntural pensamos que ciertamente

pero la crisis es más que mera coyuntura e intentaremos mejorar otros elementos que van counidos en cierta manera la argumentación que hoy ha seguido el señor casanova está dando pie o

aval a este planteamiento que yo estoy haciendo desde esta tribuna

y nosotros actuaremos sobre todo el conjunto de elementos y cada día estoy seguro que estaremos más cerca de darle solución la segunda parte de la cuestión el gobierno vasco se pone de perfil a usted le gusta mucho decir también

mutis por el foro bueno el papel del gobierno vasco para mí sin embargo es otro no este gobierno no

uno de los cuales impacta directamente en la materia de nuestro debate de hoy reactivar la economía y el empleo parte esencial de esa reactivación es hacer todo lo posible por no perder ni un solo empleo mantener todos y cada uno de los empleos es casi una obsesión y para ello está desarrollando una estrategia basada en el mantenimiento y el impulso de la industria avanzada

y la internacionalización este gobierno está comprometido con diez objetivos de país de los cuales los tres primeros tienen relación directa con lo que hoy debatimos

drástica del desempleo superación del cuarenta por ciento del pib en la industria y en servicios avanzados

concretos compromisos que se despliegan en ciento dos iniciativas la mayor parte de las cuales ya están en marcha principios estrategia objetivos de país compromisos

de perfil o a ponerse de perfil efectivamente como comentaban

debatíamos sobre la crisis de la industria aeronáutica

en aquel momento hoy aprobamos un texto que no es copia y pega de nada es un texto similar

similar ya lo ha dicho el señor rico también y yo me alegro de que usted vote a favor de ese texto de nuestra enmienda como ha anunciado

recoge la esencia del programa de gobierno un programa de gobierno que da eficaz respuesta a muchas de las situaciones

a modo de ejemplo en la comisión de trabajo que también se ha recordado del pasado once de mayo el presidente del comité de empresa de tubacex

nos acompaña se mostraba preocupado además de por la situación de su empresa

por la situación de toda la comarca es una situación preocupante la de la comarca nos decía y nos hablaba de la necesidad de que la comarca coja aire es una preocupación compartida

compromiso programático zonas de actuación prioritaria y empresas en dificultades compromiso diecisiete página cuarenta y tres ahí está es un compromiso

como decía antes la antítesis de ponerse de perfil esto es liderar la recuperación económica del país desde el gobierno

señor casanova parece olvidar hoy ha olvidado en su intervención el diálogo el diálogo social es un elemento transversal metodológico que da sentido a toda nuestra realidad

este gobierno tiene un compromiso esencial con la profundización en el diálogo social con el impulso de la negociación permanente entre los agentes económicos y sociales y con el refuerzo del sistema vasco de relaciones laborales la mesa de diálogo social sirve de impulso y motor a la negociación colectiva

en todas esas empresas este elemento es la esencia del texto que nosotros presentamos en el día de hoy

ha recordado el señor rico y nos alegra que se sumen a este texto diálogo negociación

un elemento esencial como le decía que usted a veces

pero recopilando algo más que coyuntural y usted también en cierta manera lo reconocía gobierno liderando

pero quiero hablar también de un cuarto elemento la asimetría y no es la asimetría que usted piensa que le voy a decir me refiero a la reforma laboral

en aquella comisión que nos decía la famosa reforma laboral y creo que también nos corresponde dirigiéndose a los grupos parlamentarios

esa reforma laboral afecta muy claramente a tubacex decía seguramente que ya lleguemos tarde en tubacex pero es que después de tubacex puede haber otra empresa y otra

efectivamente la negociación colectiva en euskadi se ha devaluado de manera importante con la asimetría que impone la reforma laboral del dos mil doce

y de empresa acompañada también de un bloqueo

entre los agentes sociales y empresariales que se traduce en dejar sin cobertura en la actualización de las condiciones contractuales a un importante colectivo de trabajadores

solo ha podido ser revertida con la reactivación del diálogo social quedando por delante un inmenso un importante trabajo por realizar en este ámbito que nos queda un

en este ámbito de la reforma laboral usted tiene iniciativa en esto

resulta de vital importancia continuar reforzando el sistema vasco de relaciones laborales y fortalecer el consejo de relaciones laborales y la mesa de diálogo social diálogo y negociación permanentes como las herramientas que permiten encontrar la solución a los conflictos laborales abiertos y proteger los derechos de las personas trabajadoras

a los trabajadores de tubacex que nos acompañan un abrazo y nuestra fuerte solidaridad por su situación

y de la mejor manera posible la verdad es que están en un sector complicado

y el señor casanova acaba de reconocer en la última parte de su intervención el sector de fabricación de tubos está sufriendo un cambio estructural a nivel mundial provocado

que viene desde dos mil catorce consecuencia de la necesaria transición hacia la descarbonización de la energía

y el desarrollo sostenible son afortunadamente una tendencia irrefrenable en la economía mundial prueba de ello son las enormes inversiones en energías limpias que empresas como repsol total bp etcétera han comenzado a abordar pero que conlleva necesariamente la reducción de sectores enteros como el de fabricación de tubos no es posible

de tal forma que esta crisis no afecta solamente a tubacex a todas las empresas que operan en este sector como todos sabemos y es verdad que a esta situación que viene de lejos se le ha acumulado recientemente la crisis económica derivada del covid

en todos los sectores provocando una fuerte caída de la demanda pero pretender que los problemas del sector de tubos se deben exclusivamente a la pandemia es no querer ver la realidad porque no nos conviene en este contexto las ventas los datos objetivos las ventas de tubacex en dos mil

millónes de euros un veintiuno coma ocho por ciento menos que en el ejercicio anterior y el ebitda se ha situado en treinta y ocho coma uno millónes de euros un cuarenta y tres coma dos por ciento menos que en dos mil diecinueve

ha sido veinticinco coma tres millónes de euros de pérdidas concentrado en gran medida en las plantas vascas como consecuencia

a tomar la decisión de reducir la plantilla en torno a un veinte por ciento a nivel global para ajustar su dimensión al descenso de la demanda internacional y con el objetivo de asegurar y de garantizar la sostenibilidad del grupo además de otras medidas que han tenido que tomar

y esto ha generado noventa y cuatro despidos forzosos a través de un ere

en proceso judicial ya que los sindicatos han reaccionado con una huelga indefinida desde nuestro grupo parlamentario lamentamos mucho que la situación haya llegado hasta aquí y que esto esté como está comprendemos perfectamente lo mal que lo estarán pasando

como el resto de los trabajadores de la empresa que ven peligrar su puestos de trabajo y desde aquí repito les transmitimos nuestra comprensión nuestra cercanía y nuestro deseo

más satisfactoria posible para todos lamentablemente tendremos que esperar a la resolución judicial para ver cómo acaba este tema y mientras tanto

consideramos que no hay que utilizar políticamente este conflicto ni tampoco tenemos que echar más leña al fuego por ello pensamos que esta propuesta no tiene mucho sentido

imponer a una empresa privada la retirada de un ere que en última instancia es un instrumento empresarial de flexibilización de plantillas ante los cambios de la demanda que tiene como objetivo salvaguardar al resto de la plantilla

están perfectamente reglamentados y su correcta aplicación es competencia de la inspección laboral y en última instancia de la justicia

y hay que respetar los unos y los otros también pensamos que este parlamento tampoco debería pedir al gobierno vasco que asuma las reivindicaciones de una de las partes

que su responsabilidad es crear las condiciones socioeconómicas adecuadas para que los ciudadanos tengan las mejores oportunidades posibles y las mejores coberturas sociales cuando estas se pierden

tiene una especial relevancia tres ejes de actuación que constituyen la clave de la generación de riqueza y empleo para el futuro la formación la investigación y el emprendimiento las políticas de formación que permiten

creemos que hay que invertir más en formación para rescatar a las personas que se ven atrapadas en los cambios tecnológicos y sociales imparables de la sociedad actual

en la carrera por la competitividad con otras regiones europeas y mundiales y junto a la formación

porque la investigación es un eje generador intrínseco de valor que necesita el mayor impulso posible de nuestra sociedad y de nuestras instituciones y la tercera pata de este trípode es el emprendimiento

el plan de emprendimiento porque sin empresas

sino las empresas ninguna empresa

forma y cuida y para que euskadi progrese necesitamos más emprendedores más empresas y más inversiones y nadie

de alta conflictividad social no lo haríamos tampoco nosotros por eso necesitamos evolucionar hacia un nuevo modelo de relaciones laborales y sindicales en el que el conflicto no sea el objetivo no sea la estrategia no sea la costumbre sino un nuevo enfoque

orientado a ganar ganar en el que todos los agentes tengan claro

es la supervivencia y el desarrollo de la empresa condición imprescindible para la generación y el mantenimiento del empleo y que para ello la negociación en la búsqueda de acuerdos no maximalistas

con el conflicto de tubacex consideramos que dado que el caso está en manos de la justicia

sin interferencias políticas y esperamos que pronto se alcance una salida justa que permita abrir una nueva etapa en la vida de todos los afectados muchas gracias eskerrik asko gil jauna

turno de réplica si usted está a favor o en contra del ere está usted a favor de que se retire el ere está el pnv a favor de que se retire el ere de tubacex responder a eso en un sentido u otro es no ponerse de perfil es dar la cara creo que haría una gran contribución a este debate

y retrataba mucho a los políticos de la transición todos muy serios con corbata

no la repito aquí por casualidad ni por forges la repito porque precisamente en estos momentos la diferencia entre que un despido

precisamente es si las cosas son coyunturales o estructurales por tanto no es ni una fijación semántica ni una

sino que realmente estamos hablando de lo que todo el mundo está hablando en los comités de empresa en los tribunales laborales y en todos los lados si hay causas que justifiquen los despidos en esta situación o no y si es un problema coyuntural relacionado con la pandemia en ese caso es que no se puede despedir porque se ha hecho una legislación específica ad hoc para que no se pueda despedir repito antes voy a leer algún extracto de la sentencia que declaraba nulos los despidos de itp pcb antes hablaba de lo de la criogenización

que es un instrumento válido evidentemente y muy afectado precisamente por la reforma laboral como usted decía pero es que en este contexto en esta coyuntura un tribunal

y se ha asumido por el legislador una función propia de los interlocutores sociales el legislador es usted señora mendia y es usted señor rico el legislador que ha hecho precisamente en madrid el que ha hecho decretos y el que ha hecho leyes

es el partido socialista que aquí también se ha puesto un poquito de perfil porque yo creo que en este parlamento tenemos que perder o tienen ustedes que perder un poco el miedo a mojarse que a veces le tienen más miedo a mojarse que un gato al agua mójense en ciertos temas que una cosa es y el lehendakari nos lo ha recordado una cosa es el gobierno y otras son los partidos bueno pues como partidos

aquí están frenando entonces si en este caso tienen otra voluntad busquen los límites

que dice por ejemplo que todo el bloque normativo dictado para la pandemia forma un conjunto holístico y sistémico

en un rango efectivo similar al de la protección de los derechos fundamentales

y luego han cometido otros muchos errores y en otras cosas han acertado las cosas como son pues sean coherentes y aquí también

porque es mucho lo que está en juego sobre la resolución que han presentado

objetivas y que se pueden contrastar si habla de las empresas del sector y estamos hablando de una única empresa

que todo el mundo hace si creen que es pertinente responder de la misma forma y de hecho a nosotros no nos parece impertinente del todo hasta el punto que bueno no es lo que nos gustaría es bastante regulinchi pero algo es algo nosotros no hubiéramos firmado

si aquí se tratará de responder a toda la problemática del sector simplemente remitiéndose a esta cuestión de la negociación colectiva como se hizo en su momento que el sector aeronáutico porque el sector tiene otra serie de problemáticas pero con respecto a la situación de se puede considerar como válido eta sektoreaz hitz egiten

aldaketak pero si vamos a la narrativa de la empresa y a lo que ha ido proyectando durante estos últimos años a través de sus redes sociales su página web y demás vemos cómo hasta hace bien poco era una empresa que vendía solvencia que vendía que no había ningún problema que vendía que tenía doscientos millónes en caja

de hecho lo sigue diciendo y que no tiene ningún problema de viabilidad y ahora empieza a decir que con estas plantas no puede mantener el grupo

que efectivamente se está apoyando en unas pérdidas de unas plantas que son coyunturales que además

tiene un margen de discrecionalidad bastante importante y como vemos que hay una obsesión por construir una narrativa que reprocha a estos trabajadores y trabajadoras haber conquistado derechos pues lo que nos tememos es que precisamente lo que se está buscando es precisamente recortar

y parece que estoy redescubriendo américa pero es que esto es una práctica

cada uno en el marco de sus responsabilidades tiene que denunciar y ya le digo si se quieren dejar de poner de perfil pues adelante rechacen el ere y pidan a tubacex
eche para atrás y que readmita a los despedidos eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

es algo que está empleando los trabajadores es algo que también

se está hablando en esos juicios pero hay una cosa que para desde luego para nuestro grupo es importante cuando miramos a este conflicto porque es un conflicto no son artificiales surgen de cuestiones materiales concretas y es algo que yo he intentado también introducir en mi intervención anterior estamos hablando de una empresa que ha ganado muchos millónes hasta hace tres días que ha ganado mucho dinero y por lo tanto a nosotros desde luego

que trajimos en su momento nos parece absolutamente

el planteamiento de despido colectivo de más de cien personas en una empresa

que unos meses antes de este planteamiento estaba ganando millónes de euros nos parece absolutamente obsceno si es un problema estructural las cosas se plantean

las apelaciones a la negociación colectiva que han hecho el señor señor rico desde luego

que acordamos además la iniciativa nuestra que trajimos pero es que en este caso a mí me parece además

es que la negociación colectiva ya se ha dado es que esta misma semana las juezas han propuesto

una negociación en un acto de conciliación donde además también no sé exactamente qué tipo de acto pero la conciliación laboral requiere también de una mediación

a la que se ha referido el señor rico también

no quiere negociar no quiere negociar nada quieren acometer los despidos antes de que llegue la reforma laboral

ya qué quiere que le vuelva a decir porque usted ha hecho referencia me ha mirado

usted se ha referido a mí quiero decirle también en tono de broma porque me da la sensación que a veces considera usted que yo soy el ministro de trabajo usted ya sabe nuestra posición usted ya sabe lo que se está haciendo y efectivamente desgraciadamente para los trabajadores de tubacex

que llegue tarde usted ya sabe perfectamente nuestra posición para acabar con esa reforma laboral yo conozco la suya

y seguro que el pnv estará a favor de la misma no le voy a reprochar a usted lo que vayan a hacer en el futuro usted ya me lo ha dicho más de una vez quiero decirle que ahora mismo

de apoyo a los trabajadores traída por los trabajadores pues bueno efectivamente ahora nosotros lo que les pedíamos porque nos lo pedían los trabajadores es que le digamos a la empresa una cosa porque yo discrepo mucho del señor gil vegas yo sí creo que los parlamentos están para hacer ese tipo de declaraciones

igual que usted plantea aquí que hay que ir a otro tipo de modelo de relaciones laborales y que algunos grupos aquí les dicen a veces a los sindicatos cosas que igual a los sindicatos no les gusta oír

de algunas patronales y de algunas empresas en algunas ocasiones claro que sí para eso está también la política y para eso están también los

un nuevo modelo de relaciones laborales no va a acabar con los conflictos señor gil vegas los conflictos

los conflictos laborales son producto de realidades materiales concretas los modelos de relaciones laborales podrá facilitar

en un mundo donde los medios de producción son de unos

las empresas crean riqueza porque tienen trabajadores las y los trabajadores son los que crean la riqueza las y los trabajadores de tubacex son los que han permitido que tubacex gane mucho dinero o mejor dicho las y los trabajadores de tubacex incluidos los ciento veintipico que se van a quedar en la calle si pierden el juicio

hayan ganado mucho dinero eso es un conflicto de clase que no se produce porque un sindicato tenga determinadas estrategias

producto de la realidad material de la vida eskerrik asko hernández jauna

a la enmienda es algo que no termino de entender se nos dice que nos ponemos de perfil con nuestra enmienda y nos va a votar a favor

por ciento de este parlamento pues igual es que no nos hemos puesto tan de perfil igual es que en esta enmienda reconózcalo se dicen cosas que son bastante importantes yo creo para los trabajadores y para las trabajadoras

de la que me alegro porque más allá de mostrar la solidaridad y el deseo de que pronto puedan ver resuelta la trágica situación que están viviendo yo creo que

de coherencia y en este mismo periodo de sesiones nos estamos encontrando con diferentes empresas con diferentes sectores que están envueltos en una situación de crisis y a nosotros no nos resulta coherente plantear recetas distintas a cada tipo de conflicto cuando la base sea la misma y en este caso

despidos lo que hace dos meses era una buena transaccional con elkarrekin podemos hoy también es una buena enmienda para esta situación porque si recuerdan aquel debate hablábamos

absolutamente de lo mismo por eso es buena esta

no nos ponemos de perfil y por eso como les he dicho en mi primera intervención nosotros compartimos que con carácter general frente a la situación

y la adaptación a los nuevos retos y siempre con el objetivo principal del mantenimiento del empleo y de evitar la precarización de las condiciones laborales y eso se recoge en la enmienda y eso no es ponerse de perfil y con nuestra enmienda también ponemos en valor

aquí en más de una ocasión y en la enmienda llamamos a empresa y trabajadores a que busquen soluciones alternativas a esos despidos que consideren fórmulas coyunturales que eviten despidos y que permitan la readmisión de los trabajadores

y esa declaración de este parlamento es muy potente es muy potente en estos momentos el proceso está judicializado lo saben pues bien nosotros llamamos a que se sigan explorando

que ojalá lleven a la retirada del ere como fruto de ese diálogo entre las partes y señor casanova nosotros nos mojamos claro que sí y el gobierno vasco

se moja no nos ponemos de perfil y

empleo y trabajo ha habido contactos con ambas partes para

mediación pero con la legislación laboral en la mano solamente si lo solicitan las dos partes se puede hacer y no lo solicitó ninguna de las dos y eso también hay que contemplarlo

y con el resto de administraciones públicas y siempre como he dicho con ese objetivo de mantenimiento de empleo y condiciones laborales

nosotros hoy además de reiterar nuestra solidaridad y el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de tubacex encima de la mesa las actuaciones concretas que serán las únicas que permitan la resolución de este tipo de conflictos y en cualquiera de los sectores afectados por la crisis el mantenimiento del empleo de sus empleos pero más allá de cualquier declaración eso requiere de diálogo entre las partes acompañamiento a las instituciones en el mismo

y arraigo que defendemos y más allá de discursos agradecer que la enmienda que hemos propuesto hoy sea aprobada por el noventa por ciento de esta cámara

a mi juicio muy importante en el debate de hoy el tono creo que con este tono y con

de este debate hemos podido aportar algo positivo estoy convencido que hemos podido aportar algo positivo en vez de aportar algo negativo a esta situación y con su

de las votaciones pero me parece importantísimo recalcarlo señor hernández ya sé que usted no es la ministra de trabajo ya lo sé

sí creo que es importante sí creo que es importante recordarle

cumplimos aquí cada uno y referido a esta cuestión que nos recordaban y que yo le recordaba y que usted también recordaba es decir la reforma laboral yo sí quiero recordarle que con excepción de la de mil novecientos ochenta a nosotros siempre nos ha parecido como formación política que eran reformas

a peor claramente y respecto a la vigente tenemos clara postura no nosotros consideramos que pervirtió un elemento esencial

la negociación colectiva como clave de bóveda en la configuración de las relaciones laborales deslizando

facultades de negociación e imposición que a nuestro juicio desequilibraron los sistemas de convención colectiva eso es

esa asimetría con lo cual ya sabe cuál va a ser nuestra postura respecto

traigan esa cuestión o que se traiga

en todas presentaremos nuestras enmiendas respecto a lo que comentaba el señor casanova

con el texto de nuestra enmienda y para quitarle ese carácter de despectivo

lo que he querido recoger aquí es no es un corta y pega porque

yo entiendo que un texto corta y pega tiene un elemento quizás despectivo y a nuestro juicio ese texto que nosotros defendemos no tiene ese elemento

tiene el elemento de hacer un análisis de una situación y es un análisis que se corresponde también

porque no era nuestro texto inicial y derivado de un proceso de negociación aprobamos ese texto me dice respóndame usted a esta pregunta respóndame a esta yo sí tengo posición sobre

yo sé qué papel cumplo dentro de una institución pública como sé qué papel cumple el gobierno

cumple el gobierno también viene recogido en nuestra enmienda el gobierno cumple un papel lo ha recordado también el señor rico

se lo voy a leer para que quede claro que fue muy crítico con este papel

en el anterior debate cumple un papel

un mantener abiertas todas las vías de diálogo ese es el intentar mantener abiertas todas las vías de diálogo porque esa es esa función del gobierno o lo que le ha recordado el señor rico su papel de mediación en el conflicto claro una mediación que viene dada por quién viene dada

por la voluntad de los titulares de las relaciones laborales y hay una cuestión que a mí me llama la atención usted se empeña y se empeña mucho a mi juicio

no es un titular de las relaciones laborales los titulares legítimos de las relaciones laborales son los representantes de las y los trabajadores y la empresa

y esa irresponsabilidad y si usted juega a eso está jugando de una forma irresponsable eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

señor hernández es evidente que usted y yo tenemos

muy diferentes sobre cómo funciona la economía sobre cómo funciona la empresa y sobre cuál debe ser el papel de los diferentes agentes sociales y no creo que vayamos a convencernos

de que aquí no cambiaban las creencias de nadie aunque resultaba divertido debatir con usted las veces que haga falta y en el foro que haga falta contrastar estos puntos de vista porque seguramente será enriquecedor para ambos pero

de cambio mire únicamente con el único afán de poner datos encima de la mesa en la medida en la que pueda ayudar a clarificar el discurso como usted ha hablado de los

vamos a ver cuáles han sido desde el dos mil catorce he dicho antes empezó más o menos la crisis del sector en el dos mil dieciséis que son los primeros datos que tengo tubacex tuvo cero coma cinco millónes de euros de beneficio casi casi a cero en el dos mil diecisiete tuvo unas pérdidas de diecinueve coma siete millónes

esto no era del covid obviamente por decirlo todo en el dos mil dieciocho tuvo diecisiete coma cuatro de beneficio

obtuvo once coma uno millónes de beneficios y en el dos mil veinte como ya hemos dicho ha tenido veinticinco coma tres millónes de pérdidas

pero más allá de todo esto hay una realidad que creo que hoy no debemos que entiendo yo que de perder

los trabajadores de tubacex que están pasando por una crisis y por una situación lamentable la realidad es que están en un sector que está cambiando y está cambiando además

y eso es lamentable pero lo que tenemos que hacer es ayudar desde aquí a que nadie se quede tirado

y que son irremediables porque tienen que ver con la evolución global de la sociedad sin más